kudeaketarako zerbitzuan efectivamente señora consejera ya hace meses que empezamos a escuchar que el departamento de seguridad tenía intención de reorganizar el servicio de apoyo a la dirección de atención de emergencias y meteorología conocido con el acrónimo de sadae tratándose de un servicio de apoyo y gestión de las incidencias y de las emergencias que se derivan de las llamadas recibidas en el

parece que alguna lógica ha de tener la propuesta ahora bien una cosa es atender las llamadas telefónicas desde un único servicio ubicado y organizado en una sede como la que dispone el departamento de seguridad

bien diferente la atención in situ de las incidencias que se producen y se comunican a través de esas llamadas y evidentemente hacerlo con la máxima eficacia

importante para esa atención localizada y urgente de la emergencia sea cual sea su carácter tanto si es policial de tráfico sanitaria

o cualquier clase de emergencia por eso le preguntamos hoy los motivos por los que han decidido unificar ese servicio en txurdinaga a qué responde es decisión

cuál es la aportación efectiva de la reorganización del servicio sadae a la mejora de la calidad en la atención de las emergencias en euskadi

legebiltzarkideok egun on lo primero que quiero puntualizar es que el equipo

una sede que como usted indicaba señor latxaga desde dos mil doce exactamente centraliza el servicio de atención telefónica

emergencia pero también alberga otros servicios de la dirección de emergencias como es el servicio del personal técnico de intervención y también servicios de la dirección de tráfico como es la atención al once

incluye al personal que vela por el buen funcionamiento de los procedimientos de coordinación en la atención a emergencias constituye por tanto el eslabón esencial en el momento inmediatamente posterior al que se recibe una llamada en el

es un servicio por tanto imprescindible para una adecuada valoración de la emergencia análisis de la información que se recibe y lo es también para una coordinación eficaz y para la movilización adecuada de los servicios que se precisan

de las situaciones lo que pone en valor que la gestión operacional de la emergencia esto es que los servicios del

el técnico o los servicios técnicos de intervención compartan un mismo espacio compartan sinergias trabajen juntos en el centro de coordinación de txurdinaga porque de esta manera el tercer nivel de atención

el incidente o la emergencia el que se ofrece territorialmente es decir el de bomberos

recibe un mayor y mejor apoyo desde sadae por tanto la reorganización de este servicio del sadae el servicio de apoyo a la dirección de emergencias

en términos de eficiencia en términos de mejora de los procedimientos de coordinación y también de la capacidad de respuesta ante situaciones ante

han dagoela oraindik y no se confundan de adversario político el problema

con madrid incluso con su propio socio de gobierno en este momento con el partido socialista que no ha cumplido

y las que anunciaron para julio pues no sé dónde van a estar yo me temo que nos quieren y nos tienen paralizadas eta esango dizut euskal herria bilduren jarrera oso argia izango da

paralisi fase batean gaudela porque es evidente que al pnv le va muy muy bien en su estrategia electoral pero es una estrategia desde mi punto de vista preocupante para este país

los votos en los caladeros del partido popular y del partido socialista

es así como engordo la bancada del partido nacionalista vasco básicamente

les va muy bien pero creo creo en todo caso

y yo digo que acuerdo sí pero en base a un proyecto en clave de país tienen la mano de euskal herria bildu tendida para llegar a acuerdos en los presupuestos para hablar de demografía para hablar de empleo de calidad

tienen la mano de euskal herria bildu tendida para impulsar el texto articulado del nuevo estatus que como usted y yo sabemos está bastante paralizado

político y social nuevo y para avanzar para avanzar es imprescindible remplazar el actual esquema de subordinación con españa y ustedes lo saben perfectamente por eso pregunto
con el mapa de resultados en la mano van a tratar de difuminar el color que se ve en euskal herria o vamos a tratar de avanzar como país eskerrik asko eskerrik asko

reconocido que ustedes han rechazado durante más de tres décadas aquí ha habido

y logrando sacar este país adelante trabajando en las instituciones en las empresas y en la sociedad los resultados de país son positivos

pero esas aspiraciones no pueden ocultar la responsabilidad de responder con realismo a los compromisos del día a día el realismo que usted mencionaba que construyen sociedad y nación y esta es la exigencia de la ciudadanía y esa es nuestra tarea

activar las herramientas que tenemos y tratar de lograr nuevas herramientas ustedes pueden seguir mirando la caja de herramientas o pueden comenzar a utilizar esas herramientas aquí hay posicionamientos del once de abril también

euzko abertzaleak en cuanto al cumplimiento del estatuto de autonomía eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

las leyes de cambio climático para cuándo la de movilidad sostenible

tendrá que demostrarlo marcando esta ley como prioritaria

de estas leyes va a depender en gran medida el modelo productivo de euskadi de las próximas décadas y de la articulación territorial leyes que deben de abrir un debate urgente que su retraso solo suponen que euskadi este perdiendo el tren de la oportunidad

para estas fechas las tres leyes del departamento de empleo y políticas sociales deberían estar ya en el parlamento y no están ni la ley reguladora de lanbide ni la ley de rgi

estamos hablando de tres áreas fundamentales de nuestro sistema de protección social y de bienestar son estas leyes las que tienen que preparar el sistema para proteger y dar seguridad a las personas cuando vengan mal dadas pero nos da la impresión

llevan cinco meses quejándose de que la oposición no apoya sus iniciativas

el gobierno en dos mil diecinueve la de acompañamiento presupuestario salió adelante con la abstención de elkarrekin podemos el balance

es cero su gobierno debería haber traído siete leyes en dos mil dieciocho y cinco el primer cuatrimestre de dos mil diecinueve cuándo las van a traer las van a traer

la legislatura yo le voy a ser sincero no tengo ninguna confianza en que las leyes que no se han traído al parlamento vayan a aprobarse esta legislatura

para los derechos de las mujeres y para la protección social entonces yo lo que le pido

haga su trabajo que comience a negociar en serio y con objetivo de llegar a acuerdos en las leyes abiertas por lo menos eso que se negocie en serio lehendakari

el programa legislativo del gobierno vasco contempla remitir veintiocho proyectos de ley a esta cámara hasta la fecha hemos remitido diecisiete proyectos y diez más están en fase de tramitación remitiremos los veintiocho comprometidos señor martínez estamos cumpliendo lo comprometido

doce como proyectos de ley y cinco como proposiciones de ley de los dos partidos que apoyan al gobierno formato convenido ante las circunstancias propias de los proyectos de estos diecisiete remitidos señor martínez el parlamento ha aprobado siete leyes el resto se encuentran en trámite aquí en el parlamento

centros de culto régimen de subvenciones modificación de la ley de igualdad incluyendo la erradicación de la violencia contra las mujeres movilidad sostenible gestión documental integral juventud cuerpos y escalas de la administración

y administración ambiental en todos los casos contamos con la opinión de los sectores afectados y en algunos casos nos han solicitado como usted bien sabe

nos han solicitado tiempo para realizar sus aportaciones lo aceptamos porque su participación es fundamental por último se han iniciado los trabajos previos de otros seis anteproyectos desarrollo rural sistema vasco de empleo atención y protección de la infancia y la adolescencia

deporte y educación también diré que en cuanto al proyecto de ley de aportaciones por ejemplo se retomarán los trabajos una vez constituidas las nuevas juntas generales

tal y como los escenarios que afectaban a diputaciones y municipios de forma previa al proceso electoral así lo aconsejaban desde hace tiempo

el calendario previsto señor martínez el compromiso del gobierno insisto es remitir los veintiocho proyectos de ley al parlamento pero una vez una vez que entran aquí no son propiedad del gobierno señor martínez yo comprendo y no cuestiono

demanden tiempo para analizar debatir y aprobar leyes el ejemplo es un proyecto de ley que ha superado ya el trámite parlamentario de pleno de enmienda a la totalidad para el que se habían solicitado cuatro ampliaciones de plazo cuatro ampliaciones de plazo por los grupos parlamentarios un proyecto de ley del que ustedes han decidido retirar las enmiendas las enmiendas parciales para que no fueran aceptadas por el grupo

proyectos de ley en todo caso señor martínez que han sido aprobados después de más de año y medio de haber sido remitidos por el consejo de gobierno al parlamento en todo caso tenemos una actitud sí nosotros abierta al dialogo con voluntad de acuerdo para que los proyectos remitidos se materialicen en leyes con el mayor respaldo posible

de una ley contra el cambio climático porque entre otras cosas teníamos claro que desde nuestras competencias teníamos que avanzar en esta carrera en la que ya por desgracia

en estos dos años no habíamos encontrado un aliado en el gobierno de españa porque el partido popular desgraciadamente se dedicó constantemente a recurrir todo aquello que desde esta cámara casi realizábamos mañana se cumple un año desde que el gobierno socialista cambio la agenda en este país

moción de censura hizo posible que las cosas cambiaran en españa y dentro de esa agenda diéramos prioridad a la recuperación salarial al blindaje de las pensiones públicas

mujeres y también a la transición ecológica tuvimos una clara victoria electoral

victoria electoral también tuvimos un respaldo en euskadi a un gobierno

país a un gobierno que profundiza en esa agenda social y con ambición de elaborar con todas las comunidades autónomas aquellas leyes y aquellas medidas que entendemos que tienen que revertir situaciones que por desgracia tuvimos que vivir en este país entre los retos a afrontar

tiene un compromiso claro incuestionable como decía con la transición ecológica y con los acuerdos

autónomas pero además el pasado domingo se han elegido también nuevos representantes en nuestros ayuntamientos y en las juntas generales que son también instituciones

de esos objetivos por eso es muy importante que todas las decisiones políticas todas las posibilidades de acuerdo que se exploren permitan mantener una coherencia con esas

porque hay quienes parecen que siguen enredados en sus cuestiones cuando la tarea urgente que tenemos entre manos todos los partidos y digo todos los partidos

la extraordinaria pluralidad que tenemos en euskadi es buscar puntos que nos permita alcanzar acuerdos entre diferentes que propicien la estabilidad porque es de esa estabilidad podrá salir la consecución de esos objetivos a los que me refiero y hoy en esta cámara en este pleno de control hay varias preguntas que se refieren al

algunos se preguntan por la responsabilidad que tiene el ejecutivo a la hora de presentar sus propuestas y nosotros nos preguntamos también por la responsabilidad que tenemos los grupos de esta cámara de

dilatarlas en debates interminables y de no dejarlas macerar como ocurre con algunas de ellas la pregunta que le trasladamos hoy los socialistas señor arriola es sobre una ley concreta que ha tenido obstáculos previos que tenían que ver

que va a requerir también altura de miras por parte de todos los grupos representados en esta cámara nosotros sabemos que mientras algunos estaban centrados

no ha parado de trabajar durante estos meses y que su departamento ha continuado con la responsabilidad que le corresponde por eso hoy le pregunto cuándo prevé remitir

gracias señora presidenta señor andueza puedo decirle que el próximo martes precisamente

que va a ser sometido a ya al proceso de información pública y de alegaciones y a su tramitación administrativa tal y como se instó

confiamos en disponer de todos los informes preceptivos en el plazo de seis meses de modo que su aprobación por el consejo de gobierno y remisión al parlamento se produzca a finales de este año o principios del año que viene

necesarias para continuar con la lucha contra el cambio climático y hacerlo a partir de una economía avanzada y neutra en carbono porque el deterioro ambiental es un problema general

entre todos hay tiempo suficiente para llevar a buen puerto este proyecto de ley y también

si anteponemos el interés general a los intereses de parte

acabaron y que hay que volver a centrarse todos en abordar los asuntos

guipuzcoano y socialista vasco estoy razonablemente satisfecho pero al margen de lo particular los resultados electorales como usted bien decía

de la sociedad vasca y que los acuerdos entre diferentes son el mejor modo de gestionar esa diversidad y de progresar como nos enseña nuestra historia esta ha sido siempre la apuesta de los socialistas vascos y esta puesta se concreta en el momento presente

a los acuerdos por la gobernabilidad y la estabilidad en las instituciones lo hacemos por convicción porque consideramos que la sociedad vasca no va a progresar cultivando y acentuando las diferencias ni arriesgándose a aventuras unilaterales

en todas las instituciones de euskadi y frente a las tentaciones excluyentes

la agenda social la que pone el acento en la igualdad de oportunidades

de todas las brechas que separan a la ciudadanía porque en esta agenda social

nuestra contribución a que podamos avanzar en esa superación

y la superación de la brecha social que afecta al conjunto de la ciudadanía vasca

pero volviendo al origen señor andueza el gobierno va a cumplir a lo largo de los próximos meses

tres proyectos de ley que engloban todo el campo de protección del medio ambiente

que estamos en el gobierno por el contrario queremos abrirlos al contraste

de las demás fuerzas políticas y entidades representativas porque esto es una labor de todos

como le he dicho que el diálogo y el acuerdo entre diferentes

para dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako bosgarren puntua

buenos días señora presidenta buenos días señor lehendakari señores consejeros señorías

hay cierto interés en lo que hablemos hoy aquí esta mañana conversación que mantengamos por la expectativa que tiene la legislatura en la que estamos embarcados

en términos de las reformas que están pendientes y las leyes que se tienen que aprobar porque todos han hablado de lo mismo

me ha contestado la pregunta tres veces para cuando subo a la tribuna pero usted no se preocupe que yo tengo capacidad para poder variar

me ha contestado que evidentemente la valoración que hace del grado de cumplimiento no debe de ser del todo satisfactoria cuando ha prometido tantísimas leyes para el periodo que queda

por la fórmula de las proposiciones de ley y que se han aprobado siete

en cartera más la ley de aportaciones ya me he perdido no se sí son veintiséis dieciséis diecisiete dieciocho leyes

a mí me salía usted me corregirá que hemos aprobado siete en tres años y que tenemos que aprobar veintiocho en un año bien

porque usted tiene varias ventajas usted tiene la suerte de poder elegir claro esto es bueno

eso va acompañado del lastre la carga de tener que decidir y hay que decidir y ya no llegamos aquí le han emplazado la señora iriarte y los de eh bildu a que pise el acelerador soberanista

estatuto y emplazarles a ustedes sabe que usted es una condición que para una relación estable e con el partido popular es muy complicado y le están apretando por ese lado yo le aprieto por el lado de las reformas pero la pregunta

si es creíble que vamos a poder hacer todo el trabajo pendiente que no hemos hecho hasta ahora si no la pregunta es usted tiene alguna idea concreta de cómo lo quiere hacer y qué nos va a proponer en concreto

de diálogo o de negociación con los grupos para que nos podamos creer que somos capaces de hacer eso en el año que queda eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

sesión de la mañana hasta el momento que son veintiocho los compromisos en cuanto al cumplimiento del programa legislativo del programa legislativo presentado por el gobierno

este gobierno va a cumplir con la remisión al parlamento de los veintiocho proyectos de ley si a eso podemos sumar más iniciativas legislativas ya presentadas por la oposición o ya presentadas por el propio gobierno sumarán más de veintiocho pero en principio nuestro compromiso es el de veintiocho

la responsabilidad que afecta a los grupos parlamentarios a los parlamentarios y parlamentarias para no dilatar en el tiempo lo que puedan ser debates que puedan ser incluso hasta innecesarios

ha habido grupos que han presentado enmiendas que luego han decidido retirarlas para que no sean asumidas por el propio gobierno vasco en todo caso señor alonso la disposición del

porque parece estamos todos aquí parados mirándonos los unos a los otros y midiéndonos hemos tenido elecciones ya no hay elecciones o no

pero si usted tiene iniciativa y yo tengo iniciativa y si usted quiere plantear reformas yo plantearé la posición del partido popular abiertamente a esas reformas le voy a poner un ejemplo tenemos en el congelador

podemos negociar pero yo tengo mis condiciones y yo quiero que cambien las cosas yo negociare eso si usted incorpora una garantía social una garantía social es que todos los demandantes de empleo que cobran la rgi estén sometidos a un programa presencial de formación

no nos podemos desentender de la gente que está demandando empleo tenemos que ocuparnos de ello tenemos que garantizar que hay un compromiso social del gobierno hacia ellos hacia nosotros y como eso hay muchas otras ideas que pueden mejorar nuestro modelo de protección social o con las reformas en los ámbitos que son necesarios para lo que compartimos el impulso de la competitividad de la innovación de la capacidad de vender en el exterior de nuestras empresas eso es mejorar las condiciones de nuestros trabajadores eso es crear empleo

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso somos conscientes de las

internas y en el entorno en todos los ámbitos y sentidos hablamos y hablamos de ello además sin tapujos ahora bien no podrá negar usted señor alonso

en junio presentaremos las directrices presupuestarias del presupuesto dos mil veinte el pasado año el partido popular no quiso sentarse a negociar no quiso sentarse a negociar señor alonso cree que esa decisión ha resultado positiva para la sociedad vasca

tras mañana un año condicionado por cuestiones propias de partidos como por el escenario pre y electoral se abre sí creo yo también

creo necesario compartir una reflexión con su partido y los otros dos partidos de la oposición a pesar de los vetos que se nos han impuesto en el pasado aunque algunos ya han fijado posición en cuanto al partido nacionalista vasco concretamente en todo caso señor alonso vamos

y le recuerdo que la agenda de acuerdos para el crecimiento el empleo y el bienestar sigue abierta por parte del gobierno vasco ámbito de desarrollo humano

renta de garantía de ingresos estrategia contra la brecha salarial inversiones en educación

plan de empleo y reactivación apoyo a personas emprendedoras y formación dual reforma de lanbide programa ambiental dos mil veinte fondos de financiación a las empresas

y su evolución dependerá también de la voluntad de avanzar en un acuerdo en las directrices presupuestarias la puerta del gobierno está abierta beraz

literalki hau esanez si vivimos juntos

la convivencia no se puede imponer eta

y creo que es conocida mi objetivo ha sido siempre tratar de influir para tratar de resolver el problema contribuir a buscar y tratar de facilitar una salida dialogada negociada y acordada a la situación lo seguiré haciendo con plena convicción tal y como he hecho hasta ahora respetando dos condicionantes primero que mi participación sea requerida y segundo manteniendo la discreción que la solución de esta cuestión exige

que he planteado hasta ahora la base de partida es que el conflicto debe ser trasladado de un marco de enfrentamiento a uno nuevo de diálogo político e institucional

arazoen parte nos encontramos ante una anomalía entre comillas porque personas que se han podido presentar a las elecciones con normalidad una vez elegidas y manteniendo el mismo estatus que cuando lo fueron ahora no pueden ejercer su representación tenemos antecedentes de anomalía democrática en el orden parlamentario señor urizar y usted los conoce bien le recuerdo

cuál es la posición del propio parlament de cataluña que ha mantenido su actividad con normalidad a pesar de la suspensión de las personas citadas de las personas electas le recuero cuál es la posición de su propio partido en el congreso de los diputados

con la decisión de la mesa en relación a las personas electas y ahora suspendidas le recuerdo que ante esta misma situación se van a encontrar ustedes en el parlamento europeo

a su representación a pesar de la anomalía democrática previsible también en este caso le recuerdo todo ello porque conviene ser exigente de acuerdo pero comenzando por uno mismo nire partetik

mi actuación institucional en el marco de mis competencias con el conflicto entre cataluña y el estado la pregunta es qué hacemos cada uno de nosotros qué hacemos todos más allá de lo que hemos aprobado en esta cámara qué más podemos hacer que no hayan hecho en la propia cataluña

le he expuesto mis posicionamientos políticos y le he recordado las propuestas que defiendo para buscar salidas dialogadas y acordadas tanto para la cuestión catalana como para el problema territorial del estado le he explicado también la conveniencia de analizar la propuesta de la directiva de claridad en europa ayer mismo

la ministra principal de escocia presentó una ley de referéndum sin fecha y sin pregunta y va a proceder a remitirla al parlamento británico para que la apruebe esto es un pacto porque no cuentan con derechos señor urizar

señor urizar todo esto que le digo a usted le parece insuficiente

mire por ejemplo la actitud de sus parlamentarios en el congreso y en el senado y no veo que hayan hecho nada excepcional

la constitución para acceder a sus cargos como senadores y diputados y han seguido en sus cargos tras conocer la suspensión de los cargos catalanes en prisión

al contrario me alegro de que sigan en sus cargos como diputados y senadores de eh bildu porque creo que serán más útiles ejerciendo sus funciones que abandonándolas

por nuestra parte nos vamos a concentrar en hacer que la vía vasca funcione con realismo sin fantasías

tenemos un modelo un modelo basado en el diálogo la negociación y el acuerdo basado en la defensa de la bilateralidad que ustedes ahora asumen como propia es un modelo no exento de dificultades ni obstáculos la vía vasca va a necesitar perseverancia pero nuestro objetivo es demostrar que hay otra forma de abordar y canalizar los conflictos

esta también será una contribución basada en nuestro compromiso con la sociedad vasca y sus prioridades eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

la compañía alemana siemens la compañía multinacional siemens absorbió a gamesa y en esa ocasión hace dos años

el año pasado usted se reunió con el consejero delegado de siemens

y la consejera suscribió un acuerdo de colaboración con

para arraigar la empresa al país ya no estaba tan claro el arraigo y el compromiso hace apenas un mes

ha anunciado que saca a la venta a gamesa a

energética de siemens la saca a bolsa en septiembre de dos mil veinte y que la participación de siemens se va a quedar por debajo del cincuenta por ciento de esa compañía sigue pensando usted que el arraigo de siemens gamesa en euskadi está asegurado

no porque pusiéramos en duda cuál era su compromiso sino por continuar en todas esas actuaciones de las que les estaba hablando es decir

en su capacidad de actuación en cuanto a mejora en la gestión de todos esos proveedores y eso es lo que estamos haciendo de una forma satisfactoria

tanto desde el punto de vista del gobierno como los proveedores representados por parte por tanto si nos atenemos a la literalidad en la pregunta además de que tengamos que hablar del arraigo tenemos que hablar de qué supone ese arraigo y esas condiciones

local pero sobre todo atendiendo aquellas empresas globales que han venido a ubicarse en euskadi concretamente en el caso que usted nos comentaba nos consta

por escritos enviados de forma literal por la empresa siemens gamesa

todas sus capacidades y le recuerdo que además no es solo siemens gamesa

otras plantas que son de relevancia que es una empresa ubicada en cuanto a generación en

todo eso va a estar asociado a la nueva empresa en la que siemens no va tener la mayoría pero en una empresa cotizada con un veinte por ciento uno tiene muchísima capacidad de actuación e insisto está demostrado

su capacidad de continuar y su compromiso con este país y le voy a poner a modo de ejemplo dos actuaciones una de las cuales se ha conocido hoy en prensa a pesar de que era conocido también

y además tiene el cincuenta por ciento de otra que fue una startup que no lo es hoy como es eso es donde tenemos que continuar trabajando para que siemens tenga desde luego arraigo y compromiso con este país eskerrik asko

señora tapia todo lo que le haya escrito siemens gamesa hasta ahora a partir de septiembre de dos mil veinte

porque dependerá de quien sea dueño y no sabemos quién va a ser dueño lo mismo que era papel mojado este acuerdo de colaboración que usted firmó con siemens gamesa

en una comunicación en una publicación en un diario se dijo se escribió que el acuerdo tiene el valor especial de querer poner freno a la polémica tras la junta de gamesa y los temores

de que la sede pueda trasladarse fuera del país vasco efectivamente el único objeto de este acuerdo fue acallar las críticas y acallar la polémica es más

le pregunte no tiene ningún compromiso y yo le pregunte por escrito

a suscribir ustedes pregunté especialmente qué acuerdos específicos se han elaborado o están en elaboración a día de hoy

no existe ningún acuerdo específico elaborado en elaboración pregunté existe un calendario para la negociación y firma de estos acuerdos específicos de aquí a dos mil veinte respuesta no existe ningún calendario también está escrito esto hay nada detrás de este acuerdo de colaboración y este acuerdo de colaboración que le llamaron memorándum de entendimiento los alemanes no debieron entender nada absolutamente

yo les he dicho en alguna ocasión se lo dije al señor lehendakari hace un año que la entrada de capital extranjero no

porque el capital no tiene arraigo solo tiene intereses y la salida a bolsa la salida a bolsa de siemens gamesa tiene unas consecuencias evidentes y es

pasa del ocho por ciento a saber cuánto desde luego nunca el veinte por ciento pasa porque ninguna empresa vasca va a poder asumir

y pasa porque en dos mil dieciséis teníamos una empresa vasca rentable moderna sostenible y con futuro y en septiembre de dos mil veinte no tendremos nada y lo que me preocupa es que en este acuerdo de entendimiento en el último párrafo se decía ninguna de las partes podrá

acuerdo excepto en caso de que se produzca un cambio de control

mi pregunta es ustedes sabían que esto podía pasar cuando firmaron este acuerdo hace un año ahora sabían que esta posibilidad se podía dar
y sino por qué se puso esta cláusula nos han estado engañando señora tapia y señor lehendakari eskerrik asko becerra jauna

señor becerra la diferencia entre usted y nosotros es que usted trabaja basado en la desconfianza y nosotros trabajamos basados en la confianza en generar confianza por tanto vamos a continuar trabajando en ese memorándum de entendimiento y muchísimas actuaciones que se están llevando a cabo y que se continúan

basados en la confianza continuamos y desde luego parece usted decir que cuando alguien viene a euskadi y compra eso es malo pero cuando salen las empresas de euskadi de compras

es tan bueno una cosa como la otra trabajemos por el arraigo de todas la maneras eskerrik asko tapia andrea

la idea que están intentando vender y cuajar es la de osakidetza no es la responsable

mesedez con mentiras intentan engañar intentan engañar a la ciudadanía para mantener un modelo clientelar basado en el miedo en el engaño en el chantaje y basado en una contratación fraudulenta fraudulenta usted y el director nuevo

han blindado el espacio de impunidad con tres líneas de trabajo uno

nombramientos a las personas que pueden estar implicadas con qué fin

utilizar la política de contratación para que quede bien claro el que se mueve el que denuncia la paga y se va a la calle como han estado intentando hacer con marta macho y el resto de los anestesistas por cierto

y tres con las actuaciones realizadas lanzando un mensaje muy claro muy claro

os va a apoyar os va a defender zeren narru sendoa behar da

legebiltzarkideok sailburuak ubera anderea como usted bien dice en su pregunta

de evitar cualquier tipo de irregularidad en todos sus procesos de selección de personal y esa responsabilidad

en ningún momento del proceso que nos ocupa ni en ningún otro ni se va a eludir en el futuro se ha explicado muchas veces en esta cámara

se establecieron una serie de medidas novedosas pactadas además con los sindicatos se crearon tribunales paritarios participaba un vocal en el tribunal en representación sindical se

única persona que firmó un compromiso de confidencialidad este primer ejercicio se corregía de forma automatizada

se modificó el baremo de puntuación de los diferentes ejercicios

y otras desde el primer momento asumió la responsabilidad y el compromiso de que el proceso se celebrara con transparencia y valorando la competencia y capacidad de los candidatos con igualdad

en la situación actual entendemos que nuestra voluntad de presencia en el proceso judicial abierto muestra también este compromiso y por esta misma razón le diré que hemos recurrido por segunda vez esta cuestión

es la primera interesada en llegar hasta el final y culminar

hemos colaborado con la fiscalía con el ararteko y personarnos en la instrucción nos permitiría participar y colaborar
como hasta ahora lo hemos hecho nuestra disposición sigue siendo la misma y es máxima eskerrik asko eskerrik asko

ustedes colaborando con la fiscalía y desde luego la pregunta de dónde vienes y manzanas traigo ustedes desde el principio han estado eludiendo la responsabilidad han estado eludiendo

ubera andrea nosotros respetamos pero no compartimos la opinión de la jueza del juzgado número dos de instrucción de vitoria gasteiz

y por eso ya lo he dicho esta semana tal y como nos permite el marco legal hemos vuelto a recurrir su decisión le recuerdo

ha actuado y a nuestro entender sigue los procesos de contratación

para todos igual sin discriminación y que podamos verlo con detalle en esta cámara como usted ha mencionado y le recuerdo también que fue el propio servicio vasco de salud quien remitió a la fiscalía y al ararteko tanto los expedientes informativos abiertos como las conclusiones de los informes internos elaborados y que son estos precisamente los informes encargados al profesor jiménez asensio los estudios psicométricos encargados a la universidad de oviedo los que han sido base tanto para el dictamen del ararteko como para el texto

para promover las infraestructuras de logística en nuestro país yo he buscado la estrategia vasca de logística que se presentó en el año dos mil catorce en el salón internacional de logística de barcelona

no me ha quedado claro si fue una estrategia o una marca o ambas cosas como estrategia como estrategia

les pedí la estrategia resulta raro que una estrategia no haya sido aprobada por consejo de gobierno tampoco es la primera vez la de los pinos tampoco pasó por el consejo de gobierno

y más raro aun resulta que cuando hemos preguntado por

de esa estrategia se nos diga que no hay evaluación por lo tanto mi primera conclusión es que a día de hoy no tenemos una estrategia vasca de logística pero entonces me voy a la segunda parte me voy a la parte de si tenemos una marca porque

cuando presentó esta marca o esta estrategia o ambas cosas o ninguna de ellas en el salón internacional de logística dijo

y ha llegado el momento de ponerlas en valor de manera coordinada acentuando su carácter multimodal y generando sinergias entre ellas

entonces yo le pregunté a su departamento a ver si

no contestaron les pregunté a ver si tenían algún instrumento para poner en valor esta marca como había dicho la consejera

de los derechos de esta marca y dijeron que no claro todo eso me escama mucho y cuando uno se pone a trastear por internet se encuentra que

está registrada por una empresa privada esta registrada por una empresa privada

de que se presentara la estrategia o la marca o ninguna de las dos cosas y uno de sus socios es una sociedad de gestión patrimonial

además esta sociedad registra la marca y la marca ahora mismo

claro tenemos una marca que presenta el gobierno vasco y que sin embargo es privada es privada está en manos de una empresa privada que además está participada por una sociedad patrimonial bueno nos dicen ustedes en la respuesta que hay una asociación una federación bclm

federation que agrupa al clúster de logística de euskadi al clúster de movilidad de euskadi a la asociación de transitarios de euskadi y a la asociación

esa federación dice en sus estatutos en el artículo seis que es el órgano de apoyo de las administraciones públicas vascas

de la movilidad y la logística del país vasco es decir tenemos una estrategia que no existe una marca que está en manos privadas y una federación privada de empresas privadas

para desarrollar la política de logística del gobierno vasco como comprenderá ahora mismo tengo que ir cambiando mi talante y vuelvo a mi desconfianza anterior

yo a usted no le puedo culpar de lo que ha pasado en la legislatura anterior pero usted tiene un viceconsejero de transportes que sí estaba ahí que era el hombre que como decía la película el hombre que estaba ahí el hombre que estaba ahí

imagino que le habrá dicho como va esto pero yo le quiero decir que cuando se utiliza dinero público

dónde se mete cómo se mete en qué se mete y con quién se mete y sobre todo cuando se gasta dinero público en infraestructuras sobre todo hay que saber

cuales son los objetivos si hay una estrategia hay que evaluar si existen las necesidades y cuál va a ser la efectividad de las inversiones y claro yo me encuentro

nacionalista y socialista en el compromiso treinta y siete euskadi nodo logístico la iniciativa dos se titula literalmente impulsar el modelo de colaboración público privada basque country logistics para el desarrollo de nuevas plataformas logísticas e intermodales

que está bien claro lo que va a hacer el gobierno el gobierno lo que va a hacer es mediante una colaboración público privada que nos empieza a quedar claro cómo es que es

y la propiedad de todo lo demás es de las empresas privadas vamos a construir tres plataformas intermodales y entonces lo que nos preocupa a nosotros es

si las necesitamos o no y hasta qué punto las necesitamos y en qué medida las necesitamos el grupo de trabajo que va a impulsar estas plataformas logísticas es exclusivamente dinero público gobierno vasco eusko trenbide sarea

y adif y entonces yo le pregunto por terminar mi intervención le pregunto me adelanto para decirle

si la tenemos dónde está y en qué consiste si no la tenemos si la vamos a actualizar para tener una estrategia vamos a recuperar la marca basque country logistics o se la vamos a seguir dejando

y vamos a ir desarrollando plataformas logísticas sin ton ni son o vamos a evaluar en primer lugar cuál es la coyuntura actual y futura respecto a las necesidades de logística para luego dimensionar la infraestructura vasca de logística y no despilfarrar dinero en hormigón baldío

señor becerra como usted decía basque country logistics fue presentada en dos mil catorce

admitía o presentaba tres elementos fundamentales de la acción del gobierno vasco en primer lugar fomentar un transporte mixto y hemos sido especialmente insistentes en fomentar el transporte por ferrocarril el transporte de mercancías por ferrocarril en segundo lugar

la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte pero además todos estos principios básicos lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura desde el inicio ha sido trasmitirlos o transferirlos a planes concretos y en este caso ha sido

hasta dos mil treinta donde hemos incorporado todas estas actuaciones y

por sí mismo no define ni objetivos ni actuaciones para ello

plan director de transporte sostenible donde no solo la logística está presente sino la movilidad de personas está presente en este plan recordará que se han establecido seis

seis áreas en las que trabajar y por una parte aparece el fomento del desarrollo económico sostenible inteligente y responsable en segundo lugar el de promover la accesibilidad universal en tercer lugar impulsar ese nuevo equilibrio entre los modos de transporte que ya figuraba

potenciar la posición estratégica de euskadi en europa y fomentar el uso eficiente y responsable del transporte

integrado bueno y además para cumplir todos estos objetivos se han establecido una serie de actuaciones concretas en las que me voy a detener en primer lugar cuando queremos definir y queremos establecer que euskadi sea un lugar

que establezca una posición estratégica en todo el eje atlántico desde luego tenemos elementos que mejorar y entre ellos estamos trabajando como usted bien sabe también por el desarrollo y la puesta en marcha definitiva de lo que va a ser la y vasca como parte crucial del eje atlántico del transporte de mercancías y transporte de viajeros

utilizado en segundo lugar hemos hecho una apuesta clara por el ferrocarril como modo de transporte de tal manera que el peso de las mercancías en este momento en el transporte por carretera es

cincuenta y cuatro por ciento que existe en europa y queremos transitar hacia esos modos de transporte por ferrocarril y también desde luego transporte marítimo hemos impulsado la variante sur ferroviaria mejorando las condiciones ferro portuarias para que se haga realidad precisamente ese intercambio modal

el trasvase de mercancías desde la carretera hacia el ferrocarril los plazos han sido largos tradicionalmente pero en este momento el estudio informativo está

en exposición pública para que se puedan hacer las aportaciones correspondientes hemos realizado y hemos impulsado

arasur y en este momento entre la diputación foral de álava el puerto de bilbao y el propio gobierno vasco estamos poniendo en marcha un aparcadero ferroviario con un valor de quince millónes de euros de costo también ahí se produzca ese intercambio modal de las mercancías por carretera hacia el ferrocarril y puedan ser además transferidas hacia el puerto de bilbao

uso de ese puerto se ha puesto en funcionamiento también se está en estos momentos construyendo un proyecto fotovoltaico muy importante el más importante

de energía diferentes empresas han establecido allí sus plataformas logísticas sus elementos logísticos puede ser bridgestone puede ser aernnova gestamp también ha puesto en marcha

se han ocupado ya el noventa por ciento de las naves logísticas después de un parón muy importante que existió desde su puesta en marcha

de acuerdo insisto con esa plataforma ferroviaria y además de bilbao se ha impulsado la autopista ferroviaria entre jundiz y lil para que además de ser un elemento importante en transporte de viajeros la y vasca y todo lo que supone su inclusión en el eje atlántico también sea un elemento clave en cuanto a transporte de

de acuerdo con el gobierno del estado y con el gobierno francés para continuar desarrollándolo no solo la infraestructura sino que además

operadores de esa infraestructura ferroviaria por tanto estamos dando los pasos para poner la infraestructura y además operarla además las plataformas multimodales de jundiz y lezo

actualizados y vamos a continuar poniéndolos en marcha a lo largo de esta legislatura hemos incorporado elementos de digitalización que van ser relevantes en lo que va a ser el trasporte y la movilidad del futuro tanto en personas que quizás está más adelantado como en mercancías

señalar que por ejemplo el puerto de bilbao va a ser uno de los lugares donde se va asumir la digitalización de diferentes proyectos y que va a ser un nodo relevante en todo lo que son los puertos del estado en cuanto a digitalización y puesta en marcha de nuevas actuaciones y como usted decía desde las empresas en la que realmente creemos y en esa colaboración público privada en la que confiamos y desde luego

hemos asentado el éxito de este país durante muchos años desde basque

mobility desde ese clúster que aúna a muchísimos actores diferentes vamos a continuar trabajando para que toda esta estrategia sea

por tanto que la gestión de envíos la optimización de rutas geolocalización de productos o cualquier trazabilidad de las mercancías sea una realidad más pronto que tarde son elementos en los que ya estamos trabajando y además en los que el sector del transporte está muy implicado en cuanto a la reducción de emisiones de ce o dos

además de ese plan director de movilidad sostenible hayamos aprobado la ley de sostenibilidad energética y el plan integral de movilidad eléctrica que el transporte marítimo a través de gas licuado también lo hayamos puesto en el puerto de bilbao trabajemos por la electrificación del transporte que tengamos nuevos puntos de recarga con la empresa ibil o que hayamos puesto en marcha ese plan renove para modificación y para mejora de todo el parque de vehículos de este país en definitiva hemos ampliado lo que eran los objetivos de basque country logistics y de acuerdo con el plan director de transporte sostenible lo que hemos pasado es a

mercancías y viajeros de forma integrada este concepto engloba muchísimos aspectos que

estrategias y desde luego señalar que no son ocurrencias que son planificaciones y que son desde luego aplicación de recursos transparente y bien realizada para llevar a cabo toda esa estrategia de la que estábamos hablando le he comentado algunas

vamos a continuar ahondando de la mano de ese clúster de esa federación que se ha constituido y que ya presentó en septiembre de dos mil dieciocho su plan estratégico

aunando los intereses en movilidad de personas y mercancías tratando de dar modernidad a nuestro sector y tratando de que aunando esfuerzos podamos llegar más lejos

infraestructuras por supuesto creemos que esa es nuestra forma de trabajar las infraestructuras ferroviarias

diseñadas y desarrolladas por parte del gobierno vasco junto con el gobierno del estado en su caso pero desde luego la utilización de esos recursos la utilización eficiente tiene que ser en beneficio como usted decía de las empresas vascas y también de su mano de tal manera que podamos tener un sistema de transporte y movilidad

y muchos menos a ese del que venimos en estos momentos eskerrik asko eskerrik asko

en el tema de la logística hace falta tener una posición estratégica si para tener una posición estratégica hace falta una estrategia y no hay una estrategia vasca no la hay

no tenemos una estrategia vasca sí la tiene la federación

tiene un plan estratégico como usted ha mencionado del dos mil dieciocho al dos mil veintiuno y tienen muy claros sus objetivos lo que quieren construir lo que no quieren construir lo que quieren hacer perdóneme la expresión pero el gobierno vasco

y cuando las empresas de logística quieren tomar algo le dicen el del bote que ponga y ustedes se dedican a poner del bote pero no tienen ninguna estrategia la estrategia la tienen las empresas privadas usted me ha hablado de la plataforma júndiz foronda

bien la infraestructura y estamos dando pasos para operarla

colaboración público privada de manual de las de su gobierno yo señora consejera no puedo entender esto no lo puedo entender que ustedes

que es privada esto va a seguir va a seguir los pasos de la plataforma arasur a la que usted se ha referido con profusión y yo también me voy a referir con profusión porque yo ya le pregunté por la plataforma arasur

en dos mil diecisiete creo que en dos mil diecisiete arasur ha tenido pérdidas tiene pérdidas y seguirá teniendo pérdidas

tenía pérdidas de en torno a tres millónes de euros en dos mil trece

luego yo le pregunté y usted dijo parece que las cosas van a ir mejor la facturación de arasur sigue un veinticinco por ciento por debajo del dos mil trece dice usted estamos construyendo

en dos mil diecisiete eran nueve se ha multiplicado prácticamente por un sesenta por ciento sorprendente todo dinero público todo dinero público

dinero público completo para una sociedad la que gestiona arasur que es araba logística que es un ochenta y ocho por ciento privada

cuarenta y cuatro por ciento kutxabank y otro cuarenta y cuatro por ciento

a reiterar por si acaso sus señorías no se han enterado merlin parques logísticos es filial de otra madrileña merlin que tengo que recordar las socimi son empresas son sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria exentas de pagar el impuesto de sociedades y con un noventa y cinco por ciento de bonificación en impuesto de transmisiones patrimoniales es decir se lo están dando ustedes dando crudo a una empresa privada pero además

del fondo estratégico del suelo le han dado otros dos millónes de euros en compra de suelo y además han planteado usted lo ha dicho una planta solar de veinticuatro megavatios de potencia esa planta solar esa planta solar no va a ser de arasur esa planta solar van a ir veinticuatro empresas vascas

y van a comprarle el suelo a arasur le van a comprar el suelo a arasur porque ustedes lo han dicho por escrito ahora no tengo aquí la respuesta pero ustedes mírenlo si no van a comprar la infraestructura van a ser las propietarias de la infraestructura del suelo y de los derechos y le van a comprar a arasur el suelo para maquillarle las cuentas a arasur

que todavía no se ha empezado pero vamos a ver cómo va por ahí son como arasur estamos

hagamos un alto hagamos una estrategia veamos qué necesidades de logística tiene este país y luego con toda la confianza del mundo nuestro grupo lo apoyará pero lo que no podemos seguir es avalando como grupo de oposición que ustedes estén metiendo dinero público

sin ningún control y sin ninguna estrategia le gustará o no le gustará pero control existe por supuesto y estrategia también le comentaba el plan de movilidad sostenible es donde se definen los objetivos y las actuaciones no solo de logística sino de movilidad en su conjunto y desde luego

si estamos hablando permítame hablar de infraestructuras más en general los parques industriales los polígonos industriales los parques tecnológicos de este país

los públicos o los privados creo que los hemos impulsado entre los públicos para después uso y fomento de la actividad privada creo que eso es así ha sido un éxito está siendo un éxito y desde luego un modelo a seguir por muchos otros lugares

porque es la forma en la que tenemos que hacer qué pasa que las infraestructuras

las infraestructuras importantes de este país como son la infraestructura ferroviaria la infraestructura portuaria o la infraestructura logística la impulsa desde luego otra vez este gobierno y el gobierno del estado porque en muchas cosas compartimos y después se utiliza para mejorar la economía y para impulsar la economía y las empresas lo utilizan empresas privadas y empresas públicas y desde luego cuando estamos hablando de la plataforma

poder explotar todo ese transporte de mercancías entre júndiz y lille hay un concurso

otras empresas pero hay una empresa pública como es euskotren y una empresa

son dos cosas diferentes y no tergiverse ni quiera mezclar porque desde luego siempre que se ponen en marcha

con un análisis importante con un análisis económico un análisis coste beneficio y como usted bien sabe y desde luego me lo ha reiterado en más de una ocasión el análisis coste beneficio se hace en base a cuánto dinero tenemos que invertir para que sea una realidad qué beneficios va a tener no solo económicos desde luego lo suele señalar en más de una ocasión beneficios sociales y beneficios medio ambientales y siempre que todas y cada una de las infraestructuras que se ponen en funcionamiento y cada vez desde luego lo hacemos con muchísima más intensidad llevan un análisis coste beneficio y todas y cada una de las infraestructuras que estamos poniendo en funcionamiento así lo están haciendo

intenta poner en funcionamiento una nueva desde luego arasur lleva mucho tiempo funcionando pero hoy en día está siendo una realidad con implantaciones logísticas de empresas locales con implantaciones de todo tipo que en este momento están llevando a tener un arasur noventa por ciento ya desde luego

cosa que llevábamos mucho tiempo persiguiendo hoy en día está siendo una realidad y tenemos posibilidad de continuarlo y desde luego las diferentes administraciones tenemos que implicarnos para que esa plataforma ferroviaria que vaya a existir en arasur y que desde luego se ha incrementado en costo porque va a dar mejores servicios porque es más amplia porque tiene está preparada para los nuevos trenes no los de quinientos metros sino los de setecientos cincuenta por todas esas razones que creo que son las que de verdad tenemos que poner sobre la mesa van a hacer que arasur sea mucho más competitivo de lo que ya lo es en la actualidad luego

toda planificación también y atendemos desde luego a las necesidades que se nos plantean las que siempre evaluamos con ese análisis coste beneficio y buscamos la competitividad de nuestro sector privado por supuesto sea el de logística

hoy en día una industria no se entiende sin logística pero ayer tampoco se entendía

la materia prima tiene que llegar a las puertas de una empresa y el producto acabado tiene que salir y si no tenemos infraestructuras adecuadas para dar respuesta a esa situación y no estamos bien ubicados desde luego ese sí va a ser un motivo para que esa empresa en un determinado momento se deslocalice

a que estén bien conectadas y tengan los servicios suficientes eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa

gracias señora presidenta señoras consejeras señorías buenos días señora consejera le interpelo en el nombre del grupo popular en referencia

de esta cámara en referencia al compromiso que se refleja en dicho programa por el que su departamento se compromete a remitir la ley de modificación de la ley

el objetivo principal de esta modificación es adaptarla

en parámetros distintos a los de hace veintiuno años que es cuando se aprobó esta ley

y además da respuesta a las nuevas tendencias que

es necesario que esta ley se adapte a la evolución de la economía vasca del desarrollo de nuevas oportunidades de actividad en el medio rural y a un nuevo modelo de desarrollo territorial

en el documento donde se recoge este compromiso que contempla que son configurar un nuevo sistema de coordinación y colaboración interinstitucional teniendo en cuenta la ley de instituciones locales

mayor protagonismo y que sean garantes del cumplimiento de la ley de desarrollo rural y definir las competencias servicios la participación y la colaboración

además plantea replantear las estructuras y los ámbitos de actuación de los órganos como son landa berri

que ya ha pasado el primer cuatrimestre del dos mil diecinueve y no ha llegado a esta cámara un texto aprobado por el gobierno sobre esta modificación que estaba comprometida

además le queremos decir señora consejera que desde el grupo popular compartimos plenamente la necesidad de modificar esta ley

compartimos en términos generales esos objetivos que se

pretenden abordar en esta modificación entendemos que después de veintiuno años de su aprobación

a la realidad de este momento pero es verdad que leyendo la ley han pasado veintiuno años y se hacen referencia a aspectos del medio rural que están hoy en plena actualidad ayer hablábamos en esta cámara del

y en la exposición de motivos de esta ley se habla del desarrollo integral del espacio rural vasco

de frenar su despoblamiento atraer nuevos residentes y nuevas actividades y para ello es necesario adecuar

como la educación la sanidad la vivienda o el transporte entre otros como le decía han pasado veintiuno años y parece que estamos donde estábamos tenemos un problema que estaba detectado entonces y que seguimos con él

que es necesario articular instrumentos que permitan la proyección coordinada de las políticas sectoriales sobre una realidad que como la del medio rural

y estos instrumentos de colaboración y coordinación inter administrativa son landa berri que ya

y los tres órganos territoriales landa araba landa bizkaia y landa gipuzkoa que son

que la verdad han tenido casi nula actividad y que

no se ha cumplido nosotros entendemos que es imprescindible estos órganos de coordinación porque las políticas que se

y que efectivamente cuando se hacen normas planes

en sanidad en educación debe haber un espacio que contemple

que estos órganos son imprescindibles para coordinar estas políticas en cuanto a landaberri que fue diseñado como decía como un órgano de colaboración y coordinación interinstitucional en materia de desarrollo rural en todo aquello derivado de la ley

de aplicación de la ley de desarrollo en el artículo diez

y dice habla de dos aspectos por un lado informar las propuestas de programas de desarrollo rural previamente a su aprobación y por otro informar con carácter previo y preceptivo los proyectos de ley los proyectos de decreto del gobierno y los programas y planes de las instituciones comunes del gobierno vasco que afecten de manera importante a las zonas rurales bien por referirse de manera específica a las actividades económicas que en ellas se desarrollan o a ciudades culturales a ciudades servicios o porque dan lugar a situaciones

establecidas por dicha ley además la ley también contiene un anexo donde se enumera todos los planes de los que landaberri debe de

señora consejera cuando el gobierno vasco en su departamento dice que quiere replantear las estructuras de ámbitos de actuación de los órganos como landaberri

reducir las tareas encomendadas por la ley quiere reducir la capacidad de coordinación nosotros como grupo popular siempre hemos insistido en el pleno

quiero recordar que la ley de desarrollo rural se aprobó en esta cámara por mayoría absoluta todos los grupos apoyaron esta ley creo que fue una ley muy trabajada desde luego desde nuestro grupo el parlamentario que llevaba esta ley en esta cámara

en los distintos territorios para buscar cuál era la sensibilidad y cómo debía de desarrollarse esta ley y estos órganos sobre todo

quiero recordar que en el año dos mil ocho nuestro grupo planteó una interpelación al señor consejero al señor sáenz de samaniego sobre el cumplimiento de los objetivos de landaberri y nos decía lo siguiente

pero que sin embargo puso en duda su operatividad que su labor era mejorable que estaba dispuesto a impulsar una revisión de su funcionamiento que consideraba estéril pretender que landaberri controle todo y que cada una de las disposiciones que desarrolla el gobierno que le parecía

y dijo que del análisis del funcionamiento de landaberri se puede llegar a la conclusión de que la focalización de landaberri debe ir más a aquellas cuestiones propiamente dedicadas al sector y además entendía que reforzaría más la posición

de landaberri porque sería más creíble y nosotros señora consejera nos gustaría saber si comparte estas reflexiones

nos gustaría saber cuál es el papel que debe de tener un órgano de coordinación similar al de landaberri y qué papel le quieren dar en esa nueva

porque como le decía nosotros consideramos que es importante y que las funciones que tiene asignadas landaberri son necesarias

salió una moción que se aprobó por unanimidad en esta cámara en las que el gobierno se comprometía a elaborar un informe con medidas y mejoras para el funcionamiento de landaberri la legislatura acabó y nunca más tuvimos un documento de esas características como suele pasar en algunas ocasiones y señora consejera

el desarrollo de esta ley si va a ser posible que entre en esta

y qué papel es lo que nos preocupa van a tener los órganos de coordinación administrativa tanto los territoriales de las diputaciones como el que depende del departamento de agricultura y desarrollo rural nada más y muchas gracias

presidente andrea bueno yo creo que ha trasmitido

situación y por qué iniciábamos desde el departamento la modificación de esta ley era un compromiso de esta legislatura la modificación de la ley de desarrollo rural dado que después de tantos años tenemos que responder a las tendencias que se van produciendo tanto en lo que está ocurriendo en el ámbito rural la relación entre el ámbito rural y la ciudad y sobre todo qué es lo ocurre en políticas comunitarias y cómo se tienen que trasponer

de todo ello y además de que tenemos que incorporar decía usted temas de salud educación por supuesto temas territoriales temas de energía de consumo

comenzamos al inicio de esta legislatura bajo la dirección de desarrollo rural tratando de poner en funcionamiento un grupo de trabajo que permitiera modificar esta ley bueno desde el inicio como decía nos pusimos a trabajar considerando que además nos iba o íbamos a tener que incorporar la modificación de la pac y como todo ello iba a tener impacto sobre la nueva ley de desarrollo rural o la modificación de la ley de desarrollo rural qué éxisto se había producido en la anterior o se estaban produciendo qué disfunciones existían alguno de los cuales comentaba usted landaberri y landagipuzkoa landaaraba y landabizkaia bueno todo esos elementos que nos permitieran

lo que hicimos es analizar que materias habría que incorporar y eran entre ellos qué ocurre con todo lo ligado con las tecnologías de información y comunicaciones cómo impacta eso en el desarrollo rural no solo el desarrollo agrario que en ocasiones nos centramos en exceso sino

el sector económico como elementos de hostelería de gastronomía de energía impactan en todo ese sentido el desarrollo

rural cómo las nuevas infraestructuras que se están poniendo en funcionamiento pueden impactar también en el desarrollo rural

perdón menos suelo para desarrollo agrario y sin embargo exista mas masa forestal

bueno qué impacto tiene además el desarrollo de la red natura dos mil en cuanto a protección de determinados lugares políticas de conservación a políticas de utilización de buena utilización de ese suelo en definitiva una serie de ámbitos que analizados a lo largo de todo ese tiempo junto con todo lo que iba a ser insisto

comunitaria por qué no además los objetivos de desarrollo sostenible de la onu como impactaban todo eso en el ámbito rural

de que no era suficiente la modificación de la actual ley y que lo que teníamos que poner en funcionamiento por todas las modificaciones y todos los elementos que había que introducir era una nueva ley

modificar la ley a establecer una nueva ley de desarrollo rural bueno todo eso desde luego nos llevó a tratar de

y si bien teníamos un primer borrador no reconocíamos una buena ley de desarrollo rural realizada de esa manera y lo que hicimos era irnos un paso atrás y al primer semestre de dos mil diecisiete dibujamos un documento estratégico

en esta ley y establecimos desde luego un esquema de lo que debía ser la nueva ley y donde se hacía referencia a

y debíamos adaptar los objetivos previstos en la ley del noventa y ocho teniendo en cuenta los nuevos cambios y parámetros algo evidente que debíamos reestructurar la gobernanza buscando la implantación de una gobernanza más avanzada que actuara desde luego de abajo a arriba que tuviera en consideración el sector que tuviera en consideración todo el resto de instituciones implicadas por supuesto las diputaciones forales

una gobernanza más efectiva y además más moderna y que debíamos renovar aquellos instrumentos que nos llevaran a una acción política más eficiente más coordinada

a través también de los instrumentos financieros que se estaban articulando y que la nueva pac además

bueno todo ello nos llevó a tener ya un borrador de ley un borrador de ley que nos pusimos a contrastar con las diputaciones forales por supuesto con las

implicados y le tengo que decir que bueno este proceso está siendo desde luego muy participativo pero muy lento y nos ha llevado a tener hasta veintiuno modificaciones de ese documento lo cual quiere decir que el documento inicial tampoco era lo mejor posible con lo cual hemos ido mejorándolo y que en este momento ya tenemos un borrador

cuál es su situación administrativa este anteproyecto de ley si lo comparamos con la ley anterior tiene una serie de modificaciones sustanciales que sí me gustaría señalar y son

en que integre el concepto de ruralidad más que el concepto y que avance en ese desarrollo territorial más que centrarnos como le decía antes en lo que es el desarrollo agrario únicamente sino que lo aborda desde un punto de vista

que integre diferentes departamentos o actuaciones de diferentes departamentos del gobierno y además otras instituciones como usted bien señalaba que además actualice y redefina los objetivos generales eso está claro que después de veinte años han quedado obsoletos

es decir que establezcamos bien cuáles son las zonas urbanas las periurbanas de tipo uno de tipo dos litorales intermedias es decir que definamos de otra manera las actuales zonas

de una forma ordenada pero que no está bien recogido en la actual ley que además todos los grupos de acción local los que aparecen en el también los tengamos en consideración de una forma ya modernizada y actualizada

coordinemos y compartamos esos órganos de trabajo entre gobierno vasco diputaciones forales y que ampliemos y le demos más capacidad a una comisión de política agraria y alimentaria al ámbito del desarrollo rural y teniendo en cuenta todas sus aportaciones a lo que va a ser el futuro desarrollo del país

además desde luego el tema de landaberri lo hemos considerado de una forma especial y lo que se propone es la actuación de una forma que se está haciendo en reino unido que hemos considerado que es la más adecuada quizá a nuestras características que es lo que ellos denominan el rural proofing y que

mucho más implicada y mucho más activa que la que tiene en estos momentos y que realmente sea un órgano que tenga capacidad de actuación además de ser un órgano consultivo como

y a nivel local reforzamos también el papel de y su acercamiento a toda

de la que estábamos hablando seamos capaces de articularla de una forma mucho más adecuada y finalmente

todo lo que es el reforzamiento de diferentes instrumentos financieros instrumentos de actuación que nos permitan aplicar actuaciones más modernas que las que hemos

actualizando aquellos instrumentos que hayan funcionado de forma adecuada cómo nos encontramos en cualquier caso en estos momentos bueno el pasado día quince de mayo se incorporó a tramitagune ya este anteproyecto de ley este borrador de ley en breve tendremos ya la orden de aprobación y se pone

en exposición pública de tal manera que se puedan ir recopilando todos los

de que toda la elaboración de esos informes puede ser larga pero sin embargo nos comprometemos a tratar de acelerar todos los plazos para que antes de finalizar este año esté

ley de desarrollo rural que se propone desde gobierno con el acuerdo de las tres diputaciones forales eskerrik asko eskerrik asko tapia

sí gracias señora consejera por las explicaciones por saber cómo está el trabajo porque efectivamente desconocíamos el procedimiento que se estaba llevando

que me parece oportuno porque efectivamente cuando una ley requiere

ya no es una modificación sino que hay que considerarlo como un nuevo texto

de esos nuevos aspectos que hay que incorporar que coincidimos plenamente como le he dicho antes y de los órganos de control que hemos tenido hasta ahora me decía no landaberri era informes informar solamente no tenía dos partes tenía

eso no es informar solo sí sí son preceptivos previos y preceptivos por lo tanto era algo más probablemente y eso sí que

su propio departamento porque yo le preguntaba por ejemplo en el año dos mil diecisiete que me mande los informes que ha emitido landaberri en los últimos años y me dice no landaberri no emite informes pues

en sus documentos cuando hacen una relación de un decreto y qué informes deben de llevar

si se lo pide mucho alguien pues igual lo hacen y si no pues no lo hacen con lo cual creo que ha habido una dejadez del propio departamento de que landaberri no cumpliese con las funciones que tenía asignadas en cualquier caso es necesaria la participación en este proceso de elaboración

y de los entes que luego van a aplicar las políticas de desarrollo rural porque en la medida que participen probablemente todo será mucho más entendible

pueden tener mayor éxito las políticas de desarrollo rural porque en muchos casos si no ha habido éxito de los planes y programas de desarrollo rural ha sido por falta de conocimiento y por falta de cómo

programas por lo tanto señora consejera nos parece bien esta nueva ley lo que queremos es que llegue cuanto antes y eso sería lo interesante para poder aprobarla en esta legislatura y por supuesto que luego tenga el efecto que todos deseamos para el medio rural que es necesario que ayer lo hablábamos y lo sobre la mesa en esta cámara que el mundo rural

una decadencia importante tanto en la actividad agraria como en la población que reside en él y los servicios que se prestan y como dice la ley que se hizo hace

veían y que hoy se han agudizado y por lo tanto señora consejera es una labor importante y necesaria muy necesaria

de lo que es la ley de la situación del medio rural y de todas las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y coincido con usted en que

de actores a esta ley y existe un consenso amplio después también la tramitación en esta cámara probablemente será mucho más sencilla es nuestra voluntad desde luego que esta ley permita una modificación de la actuación en cuanto a esa mayor implicación de todos los agentes a que tengamos capacidades desde luego

aportaciones y en cuanto al tema de landaberri sí es cierto que hay

informes que pueden ser o que son preceptivos no todos pero en cualquier caso lo que pretendemos es que además puedan ser vinculantes en algunas ocasiones de tal manera que se le dé muchísima más

actuación por tanto es nuestra voluntad que esa tramitación que suele ser larga dentro del gobierno se acorte lo máximo y sea una realidad la presentación de esa ley eskerrik asko

a la que le dirijo la pregunta usted sabe bien conoce que hace escasas semanas estuvieron los señores franco y moratalla estuvieron presentes en la comisión de empleo y políticas sociales y juventud para exponernos en nombre

qué problemas tienen o a qué problemas se tiene que enfrentar ahora mismo

a los centros especiales de empleo dirigidas al fomento del empleo de las personas con discapacidad

del mercado de trabajo especialmente protegido por las características propias de los trabajadores y de ahí precisamente la cuantía de las subvenciones que reciben normalmente en los presupuestos ellos se enfrentan a una situación crítica en estos momentos nos pusieron como línea roja el mes de junio de este año por dos cuestiones están en esa situación crítica la primera de ellas por una

que ha llevado a que efectivamente se corrijan las cuantías a lo largo

y en esta situación de prórroga presupuestaria se están encontrando con

en el inicio del presupuesto que son inferiores a las necesidades que ustedes como departamento

un sesenta por ciento la primera y un cuarenta la segunda por otra parte

de este año en esa situación necesitan veinte coma cinco millónes de euros doy por hecho señora consejera que la voluntad

entonces dando por hecho que la voluntad es solucionar el asunto sabiendo de la existencia de

yo le pregunto claramente y sencillamente es facilísimo cuándo lo van a solucionar y de qué manera lo van a solucionar

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi pues como usted bien dice señor ruiz de arbulo la intención que tenemos desde el gobierno

trabajando y apoyando con las empresas y con los centros especiales de empleo yo quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer el trabajo y la colaboración

porque tenemos un objetivo común que es el de apoyar a estas personas con especiales dificultades de acceso al empleo

hemos trabajado con ehlabe para abordar la suficiencia financiera que los centros especiales de empleo

años hemos ido subsanando en el año dos mil dieciséis teníamos una partida inicial de treinta millónes de euros que se amplió

ya en el año dos mil diecisiete la cuantía que teníamos destinada a los centros especiales de empleo al mantenimiento y la creación de dicho empleo

que fueron complementados con cinco millónes cincuenta y tres mil euros

en el año dos mil dieciocho manteniendo esa misma cuantía inicial de treinta y tres millónes setecientos mil complementamos con ocho millónes

para el ejercicio del año dos mil diecinueve nosotros en el anteproyecto de presupuestos establecimos la cuantía adecuada correcta y suficiente para atender

de ley es verdad que estamos en una situación de prórroga y que por tanto en este momento tenemos que estar trabajando con el departamento de hacienda para habilitar esas cuantías

como bien decía usted del incremento del smi y también el incremento

más grave por tanto los costes todavía se han incrementado más y en ello estamos trabajando abordándolo desde el departamento de política sociales junto con el departamento de hacienda para dotar adecuadamente las cantidades necesarias a lo largo del año dos mil diecinueve para atender la necesidad financiera que los centros especiales de empleo han tenido

también tenemos nosotros esa misma preocupación pero estamos en vías de dar solución a un problema que viene ocasionado por una situación presupuestaria y por una serie de condicionantes que desde el

interprofesional afectan a los costes salariales que tenemos que hacer frente

gracias presidenta señora artolazabal voy a tener que cambiar de estrategia porque yo le hado dos preguntas muy claras y muy sencillas y usted se tira tres minutos largos para no responder le he dicho cómo lo van hacer

cuándo pueden trasladar esa respuesta a los representantes de ehlabe los representantes de ehlabe vinieron aquí porque esta pregunta ya se la habían planteado tanto a ustedes como al departamento de hacienda en su departamento le mandaban al del señor azpiazu y en el del señor azpiazu al suyo y nadie le respondía y nadie ponía una solución encima de mesa la línea roja es junio por qué

esto está hecho los centros especiales de empleo no tienen en su mayoría capacidad o músculo financiero para hacer frente a las nóminas del mes de julio yo le pregunto cuándo y cómo lo van hacer y usted no me ha respondido ni a lo uno ni a lo otro

de los salarios de los funcionarios se habilitaron los medios inmediatamente y en febrero estaban cobrando la subida necesaria

estamos en junio que empieza mañana y ustedes no han hecho nada

miles de trabajadores que saben que sus nóminas están en peligro en el mes de julio

son dos preguntas muy sencillas a ver si esta vez podemos atinar con las respuestas para dejar tranquilo a un sector que debe ser para el gobierno de las personas especialmente protegido y de momento
no lo está porque están muy preocupados eskerrik asko ruiz de arbulo jauna artolazabal andrea zurea da hitza

de alarma en ese colectivo yo creo que es irresponsable lo que usted ha trasladado porque nosotros seguimos trabajando y lo estamos haciendo

un contacto directo sabemos de las dificultades sabemos de los problemas pero también sabemos en qué situación presupuestaria nos encontramos de prórroga si

estaría atendida desde el minuto uno y dos sí que estamos trabajando con el departamento de hacienda y a la mayor brevedad posible cuando sea posible en el ámbito administrativo

cobrar las nóminas estas personas que además es una prioridad del departamento y del gobierno eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamabigarren puntua

desde el punto de vista de la natalidad de la emancipación de los jóvenes a la hora de poder implementar las políticas pero este problema no es un problema únicamente

sino que es un problema global en el que todas las sociedades avanzadas nos encontramos en lo relativo a las actuales tasas de natalidad y a la emancipación de la juventud

y desarrolladas de la unión europea como en el resto de los países el gobierno vasco trabaja en la habilitación

desarrolle cuanto antes un proyecto de vida en su emancipación garantizada por un empleo de calidad

de una administración o de un gobierno sino que las tendencias y las nuevas actitudes juveniles también

pero usted también es conocedor y sabe de las iniciativas que desde este gobierno durante esta legislatura se están poniendo en práctica he enumerado una serie de programas se han enumerado una serie de planes se han enumerado una serie de

en apoyo a las familias y a la juventud y lo hacemos con programas y lo hacemos con un plan no planes en el ámbito de la conciliación laboral y familiar tenemos ese decreto

esperemos que para el otoño permita igualar los permisos de parentalidad

estamos trabajando en el acceso a la vivienda en la formación para el empleo lo hacen también en otros países tenemos problemas pero tenemos todos que

un artículo que aparece en un medio de comunicación en el que una investigadora del consejo superior de investigación decía que los países del sur de europa

esa situación no se está dando en este momento en euskadi tenemos un problema de natalidad es un problema también que tiene que ver con los valores y con la cultura

ni de los países del sur de europa sino que países tan avanzados como los nórdicos o francia están perdiendo en este momento o están retrocediendo en este momento en estas tasas de natalidad

uno de nuestros objetivos como le he comentado es la conciliación en la vida familiar y laboral tenemos los programas

que estamos trabajando también con las empresas vascas para que las condiciones laborales de los trabajadores permitan que las jóvenes y las

hemos avanzado también en el decreto que tiene que ver con lo que es la accesibilidad de los niños de las haurreskolak la gratuidad que se trabajó

en este pleno por tanto creo que tenemos una estrategia tenemos una serie de medidas los cambios no van a venir de la noche a la mañana de este tema hemos hablado en numerosas ocasiones

poniendo las bases para que esta tendencia revierta y para ello son importantes desde el punto de vista de la vivienda desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de la conciliación

en los cuales la situación y la realidad socioeconómica es similar a la nuestra y que no estén siempre mirando hacia abajo y miren un poquito más

y que compartimos preocupaciones a nosotros nos preocupa mucho que la tasa de desempleo juvenil siga siendo el doble que la media europea y nos preocupa que el salario medio de jóvenes dieciséis y veintinueve años sean de mil euros nos preocupa que el programa de retorno juvenil del gobierno vasco en dos mil diecisiete

nos preocupa mucho que el alquiler medio en euskadi sea de novecientos cuarenta y cuatro euros y el programa

establezca en setecientos cincuenta euros el límite para recibir la ayuda nos preocupa mucho que en la última década el presupuesto precisamente en euskadi haya disminuido un treinta y cuatro por ciento nos preocupa que nuestros y nuestras jóvenes estén a la cola de europa en edad de emancipación y nos preocupa que como consecuencia de todo lo anterior la edad media de tener el primer hijo sea la más alta de europa treinta y uno coma nueve años y claro

muy preocupante lo más preocupante no es eso lo más preocupante

y datos y la falta de voluntad o incapacidad para tomar decisiones valientes que solucionen los problemas estructurales que padece la juventud en este país herri erronka dugu aurrean

es necesario garantizar empleo de calidad por ejemplo aplicando cláusulas sociales en la contratación pública

o desarrollar la ley de vivienda para favorecer la emancipación de los y las jóvenes esta

implementar desde ya ahora porque nuestros y nuestras jóvenes tienen derecho a soñar por un futuro construido desde el presente y sobre todo

pronto estaremos ante un futuro sin jóvenes y empieza a ser demasiado tarde eskerrik asko estarrona jauna

queremos invertir la tendencia no vamos a hacer cosas improvisadas tenemos un plan y lo vamos a llevar adelante eskerrik asko

sailburua legebiltzarkideok egun on recientemente hemos conocido las conclusiones del estudio sobre el índice de desarrollo de servicios sociales por comunidades autónomas

deficiencias y retrocesos en algunos puntos concretos

domiciliaria me estoy refiriendo también a que se pone de manifiesto la falta de eficiencia entre el gasto que realizan las administraciones públicas

que revierte en los ciudadanos en la prestación de servicios

en este informe que es un informe riguroso se señala que hemos perdido posiciones si lo comparamos con otras comunidades autónomas y en concreto

hemos perdido cuatro coma cinco décimas respecto al dos mil diecisiete que teníamos siete coma setenta y cinco puntos y todavía hemos perdido más diferencia con el año

hay un retroceso evidente en algunas cuestiones concretas y queríamos preguntarle sobre esta cuestión señora consejera sobre las conclusiones de este estudio

y si se plantea implementar algunas medidas concretas para
revertir un poco la situación de retroceso en algunos aspectos concretos eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea berriro como dice señora garrido el estudio al que hace referencia traslada una visión particular del desarrollo que tienen los sistemas públicos de servicios sociales en las distintas comunidades autónomas y el informe en su primer párrafo lo que dice

hemos analizado los datos dentro de esa muestra permanente de mejora que tenemos y compromiso con el sistema de servicios sociales vascos y el estudio ofrece también una visión general en la que se comprueba que la administración estatal no ha recuperado los recortes que hizo en su día en los servicios sociales y que por tanto tenemos camino por recorrer

es interesante en su lectura contiene aportaciones importantes en las que estamos realizando

pero también hay que tener en cuenta que la información de la que parte para poder realizar ese análisis es una información que no viene derivada por las instituciones vascas sino que es una información que recogen de informes de memorias y que por tanto

sí que sigue siendo un informe importante al que nosotros tenemos

con los que nosotros tenemos dudas en cuanto a su

la materia de la teleasistencia es un recurso propio ese sí lo gestiona el gobierno vasco y de ese sí que tenemos datos fehacientes de lo que hacemos según el estudio tenemos

y con los datos que nosotros contemplamos dentro del departamento ese índice de cobertura aumenta hasta el once coma treinta y tres es un ejemplo señora garrido para trasladarle

importante desde nuestro punto de vista carece de alguna información más

somos referenciales nos visitan de otros servicios sociales de otras comunidades autónomas y por tanto claro que tenemos aspectos de mejora nuestros servicios sociales son unos servicios complejos en cuando a su arquitectura institucional pero

me quedo con la idea de que seguimos siendo una de las comunidades autónomas la mejor comunidad autónoma de todo el estado hacemos un esfuerzo importante todas las instituciones vascas

trabajando para seguir siendo y recuperar esa excelencia que tuvimos eskerrik asko

bueno señora consejera yo creo que estamos ante un informe absolutamente riguroso fiable que contrasta datos

venir a decir que los informes más rigurosos son los que

pues bueno es una opinión y puede ser una actitud pero en cualquier caso creo que no es un informe que se pueda minusvalorar y que no se pueda tener en cuenta

siguiendo la frase y el párrafo correspondiente se dice claramente que si bien pierde la calificación de excelente reduce su fluctuación global en los últimos años

décimas está claro que hay puntos flojos en el sistema vasco de servicios sociales no tengo por qué recordarle cual ha sido el desarrollo de la ley de servicios sociales las expectativas en general las hemos debatido ampliamente sobre estas cuestiones iniciativas

de la dependencia las cuestiones pendientes sobre todo en una comunidad autónoma donde hay un problema de envejecimiento de la población de reto demográfico en donde claramente la prestación

servicios como es el de atención domiciliaria en donde se constata un retroceso en dicho informe

no creo que sea un asunto para minimizarlo en absoluto por otra parte también se reconoce un desequilibrio claro como le decía

una posición puede ser la autocomplacencia y como aquí bueno pues seguimos siendo los que más gastamos pero está claro que en el informe se evidencia claramente un aspecto que es importante que es la ineficiencia es decir que se gasta mucho pero parece ser que no somos

a la hora de gastar y a la hora de alcanzar una cobertura efectiva en la prestación de determinados servicios y prestaciones a los ciudadanos por lo tanto yo creo

se plantea algún tipo de medidas de cara al futuro para corregir alguna situación en algunos aspectos concretos

no minimizamos las conclusiones que ese informe dice además yo creo que son importantes las reflexiones que ahí se trasladan

que es eficiente que tenemos que mejorar en esa eficiencia porque si bien es cierto que hacemos una inversión muy importante de setecientos tres euros año respecto

que no llegan ni a los trescientos euros creo que tenemos algo en lo que mejorar

y de economía euskadi mantiene esa calificación de excelencia euskadi sigue destacando sobre el resto de las comunidades autónomas aunque evidentemente siempre tenemos aspectos de mejora y ese punto de la eficiencia es algo que nos preocupa y en el que estamos ocupados

lo destaca que también aplaude nuestra planificación estratégica

domiciliaria u otra serie de cuestiones que en la que

señorías buenos días señor azpiazu esta mañana se ha hablado mucho del calendario legislativo al comienzo del pleno han sido varias las intervenciones en las que

legislativo calendario legislativo no es una relación legislativa de proyectos a traer a lo largo de una legislatura calendario es porque llevan unas fechas y usted lleva bastante retraso con la ley de aportaciones sé que ha habido motivos para o usted lo has utilizado motivos o excusas para no traer ese proyecto de ley

dos mil diecisiete dos mil veintiuno estamos en el dos mil diecinueve

en el veinte es un poco ridículo que una ley que se llama diecisiete veintiuno sea veinte veintiuno en realidad cuando esté en vigor pero bueno hoy el lehendakari nos ha dado

de las nuevas juntas generales de los tres territorios para impulsar definitivamente o continuar con los trabajos que ya se vienen haciendo hasta ahora para elaborar ese proyecto de ley él ha obviado que supongo que también es importante que se conformen los ayuntamientos

en la elaboración de este proyecto de ley de aportaciones vuelvo aunque no he tenido éxito con la señora artolazabal a intentarlo señor azpiazu me va a decir cuándo va a traer ese proyecto

más que a debatir y a aprobar no vamos a hacer enmiendas tiene una peculiaridad en el procedimiento y por lo tanto

señor ruiz de arbulo todavía no le voy a dar una fecha concreta pero me imagino que esta pregunta

tenía usted esta pregunta prevista para el ocho de marzo y como no hubo pleno aquel día pues la ha introducido ahora de nuevo en esta sesión y he de decirle que desde entonces apenas ha habido salvo el tema electoral no ha habido apenas

para modificar mi respuesta de la que le hubiera dado en aquel momento pero en todo caso le quiero tranquilizar señor arbulo

las diputaciones forales realizan las aportaciones al gobierno vasco con total normalidad y sin ningún problema la ley

desde el ejercicio doce llevamos en prorroga siete años pero está plenamente en vigor

ilegal y además como sabe el pasado día catorce de febrero que tuvo lugar el consejo vasco de finanzas públicas en el que se dio el que podía ser el primer paso hacia la nueva ley de aportaciones en ese primer paso fue la creación

si uno o dos territorios históricos no alcanzan

con el límite actual del fondo general de ajuste el importe de este fondo tendrá como decía un límite del cero coma cuarenta y cinco por ciento de los recursos a distribuir en torno a sesenta millónes de euros

en función de sus coeficientes horizontales el acuerdo que ha suscitado esta medida ha sido unánime

vasco de finanzas integrado como bien dice usted por gobierno vasco diputaciones forales eudel sin duda una oportunidad para seguir desarrollando una nueva ley de aportaciones en las que todos los niveles nos sintamos realmente cómodos como sabe usted no es una ley cualquiera es una norma que requiere y alto consenso político e institucional

y yo pensaba que tenía este proyecto en la cabeza y que tenía una solución inmediata

político consenso político que tienen dentro de su partido o han tenido hasta ahora dentro de su partido claro

pueda llevar a cabo con otros que defienden o defendemos

siglas diferentes yo le voy a dar una idea mire señor azpiazu hay dos de los tres territorios históricos dos de las tres haciendas forales que son las que nutren de fondos al resto de las instituciones vascas tanto al gobierno vasco como a los ayuntamientos que están protestando no ahora ni desde el ocho de marzo ni desde el ocho de marzo del año pasado sino desde hace muchos ochos de marzo

en esta ley precisamente para tener que evitar tapujos como el que aprobaron este año en febrero

lo que uno no quiere poner lo tendría que poner otro a mí se me ocurre yo le ofrezco una posibilidad

en bajar los porcentajes a los que tiene que hacer frente cada uno yo le propongo una cuestión distinta ya que a ustedes parece ser que les sobra dinero bueno eso he leído en prensa porque como usted incumple la ley también y no nos trae aquí la ejecución presupuestaria del ejercicio

no sabemos exactamente con qué parte del presupuesto han dejado de ejecutar pero yo calculo que unos mil millónes en el año dieciocho como a ustedes les sobra el dinero por qué no rebajan los porcentajes que las haciendas forales

tienen que dar para sufragar los gastos del gobierno vasco si luego ustedes no lo ejecutan quizá con eso consiguiéramos que efectivamente dejaran de enfrentarse los tres territorios pudieran llegar a un acuerdo

y de inmediato nos trajera usted el proyecto de ley que pueda entrar en vigor el uno de enero del dos mil veinte eskerrik asko ruiz de arbulo jauna azpiazu jauna zurea da hitza señor

no sé por qué saca usted la impresión de que la situación financiera del gobierno es mejor que la de otras instituciones

y plasmar en coherencia la ley de aportaciones insisto trabajamos por una nueva ley y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo que haga falta para tener la mejor ley de aportaciones el grupo de trabajo técnico se ha reunido

de este año y medio y el compromiso del gobierno y de todas las instituciones es la negociación y un acuerdo sobre la metodología espero de todas formas que cuando ese proyecto llegue a esta cámara cuente con su apoyo y el de su grupo parlamentario así como también el del resto de los grupos de esta cámara

responsable de las competencias de las políticas públicas de cada nivel institucional y la financiación adecuada para el ejercicio de las mismas

socio económicas de cada territorio proporcione asimismo un horizonte de certidumbre y estabilidad al conjunto de nuestro sistema institucional una ley que debe continuar basándose en dos principios que a la postre

neutralidad y suficiencia financiera señor arbulo en ello andamos

muy valorado por la ciudadanía actualmente existen veintinueve centros públicos de enseñanza de personas adultas veintiocho en régimen de enseñanza presencial y uno de enseñanza a distancia

la práctica totalidad de estos centros todos excepto tres cuentan además con lo que llamamos círculos

centro de referencia en aras a ofrecer un servicio más cercano a la ciudadanía además han gozado y gozan de una gran autonomía de gestión y organización

al alumno y alumna como le digo un servicio público y de calidad

el número de horas por grupo no solo no se va a reducir sino que se amplía pasando de diez a doce horas a la semana en las enseñanzas iniciales o grado uno

para extranjeros pudiendo incluso llegar a ocho horas semanales

la formación se podrá impartir en los propios centros educativos ordinarios de primaria o secundaria al que pertenecen esas familias facilitando así mucho más la conciliación familiar y también estamos trabajando con lanbide un trabajo de mejora organizativa realizado desde el consenso las mejoras introducidas han sido el resultado del trabajo de contraste y debate de la comisión formada por representantes del departamento y los centros de epa

en lo que se refiere a la actualización del currículum de acuerdo a lo dispuesto en el currículum de educación

como ya le he indicado en aras de cumplir la disposición adicional cuarta del decreto doscientos treinta y seis barra dos mil quince el departamento tramitando un nuevo decreto

básica para las personas adulta y se implanta en la comunidad autónoma del país vasco dicho borrador

tanto durante el diseño del borrador del nuevo decreto para la regularización de la organización del curso se han llevado a cabo dos tipos de iniciativas

se les ha explicado y se han contrastado los cambios propuestos en las resoluciones de inicio de curso y el primer borrador del decreto en el diecisiete de enero de dos mil diecinueve reuniones de un equipo específico que ha facilitado la toma de decisiones y el debate de las cuestiones de mayor calado relativas al nuevo decreto el catorce de febrero catorce de marzo catorce de abril y la última del veinticuatro de mayo

dos inspectoras dos técnicos del departamento y el director de centros y planificación

lehentasunetako bat izan behar dute gizarte kohesioaren ikuspegitik y en tercer lugar en lo que se refiere a la reordenación de la oferta formativa reglada y no reglada y su gestión la gestión responsable y eficiente tomando como base las competencias y criterios de referencia para otro tipo de enseñanzas y los criterios de priorización

reordenación y regularización de la oferta formativa tanto reglada como no reglada de los centros de educación para personas adultas mire señora ubera

mucho últimamente y de una manera posiblemente interesada y se ha desinformado y

resumir un poco lo que se ha ido diciendo algunas de las críticas que se han trasmitido

van a tener dos años para aprobar cada curso no es cierto por cómo están configurados los cursos el alumno elige de qué contenidos matricularse para adaptar el ritmo a sus necesidades

no va a tener problemas por los años otro asunto que se menciona constantemente las horas de enseñanzas no regladas se van a limitar al cinco por ciento de las horas impartidas

y esto no cambia tanto hoy en día como a partir de ahora las enseñanzas no regladas supondrán en torno al veintidós por ciento de las horas impartidas y dentro de esas clases no regladas lo hemos hecho lo que hemos hecho ha sido diferenciar las no regladas prioritarias

estas últimas supondrán el cinco por ciento del total de las horas pero la suma de las enseñanzas no regladas

igual que hasta ahora y para mencionar otro asunto la reducción de clases que tampoco es cierto lo que hay que subrayar es que las clases se constituyen con

no es viable creo que eso es fácil de entender lo primero para ofertar una enseñanza es que exista demanda real para ello

beste aurrerapauso bat eman nahi izan dugu el pasado cinco de noviembre de dos mil dieciocho fue presentado el estudio de diagnóstico sobre la escolarización del alumnado de origen extranjero

propuesto el desarrollo de nuevas medidas complementarias y actuaciones piloto que refuerzan nuestro compromiso con el equilibrio en la composición de los centros

otras se encuentran en fase de implementación y otras en fase de planificación eskerrik asko uriarte andrea

denboran egonkortzea tenemos ejemplos en araba

entre la red pública y la red concertada de un seis por ciento de diferencia

de origen fuera de la comunidad autónoma vasca pero también tenemos zonas que la diferencia son de treinta y dos puntos entre una red y la otra tenemos el caso de ordizia que fue la última pregunta que le hice donde

el problema y creemos que las medidas que ha puesto en marcha su departamento han incrementado la brecha ha habido iniciativas ciudadanas que en este parlamento se han rechazado hay

recursos y que no pueden conseguir los resultados que se esperaría

una serie de colectivos de la escuela pública vasca de grupos directivos sindicatos

hain zuzen ere constituir en cada territorio una mesa de planificación formada por agentes del sistema educativo que evite las situaciones de segregación

otra más sería la de que en los lugares en los que se haya producido una disminución

la convivencia tiene su departamento en ese sentido

educativa de poner en marcha medidas que realmente pongan solución a este problema apustu

pero usted me ha preguntado sobre la segregación escolar

en todo caso las diferencias que hemos constatado en las dinámicas de escolarización de un territorio a otro vuelven a evidenciar que las intervenciones que se hagan desde la perspectiva de planificación

y para ello será necesaria una mayor coordinación con las instituciones locales hemos puesto en marcha una experiencia piloto de colaboración

y orientación que se trata uno de los elementos que todos los estudios indican como determinante asimismo en marzo aprobamos conjuntamente con el alcalde del ayuntamiento

y equidad en dicha ciudad estamos trabajando en un marco similar con otros consistorios de nuestro territorio solo desde la corresponsabilidad lograremos responder eficazmente a este reto

intersectorial que comprendan actuaciones en el ámbito de protección social la juventud la inserción laboral

urbanismo vivienda política lingüística entre otras como le he dicho estamos implementando nuevas medidas algunas ya dan fruto este año otras estamos trabajando para el próximo curso

como esto sabemos no se soluciona de un día para otro y estamos en un camino de largo recorrido en el que todos tenemos que colaborar eskerrik asko uriarte

informar que anualmente los módulos económicos de financiación se aprueban con la ley de presupuestos de cada ejercicio dichos módulos se calculan por unidad escolar en analogía con los costes de la enseñanza pública teniendo en cuenta los componentes de gastos de personal

el departamento ha actuado y actúa con absoluto respeto a la normativa vigente ateniéndose como no puede ser de otra forma al principio de legalidad son más de diez reuniones y contactos los mantenidos por parte de las distintas direcciones competentes del departamento de educación

desde que en febrero de dos mil diecisiete se solicitó información relativa al contenido y cálculo de los módulos de financiación de la concertación de los ciclos formativos así como información relativa a los cuadros horarios a fin de conocer el estado de situación en lo relativo a la aplicación

el departamento ha realizado un primer análisis que ha sido compartido con la organización sindical que usted cita con fecha de trece del presente mes de mayo dicha organización sindical ha presentado una reclamación

y se dará cumplida respuesta eskerrik asko uriarte andrea becerra jauna zurea da hitza

financia limitadamente a los centros concertados pero también es verdad que el dinero que sí

de alguna manera al departamento de educación le corresponde analizar y estudiar

gasta adecuadamente o no yo no me he referido a ningún sindicato porque no hay solamente una cuestión hay una que está denunciada por el sindicato ela hace ya tres años

del dinero dedicado a horas de gestión y seguimiento de las prácticas en empresas y de las horas para el segundo docente durante las prácticas hay un informe de su propio departamento que viene a determinar que podrían haber sido hasta tres millónes y medio de euros al año los que se podrían haber gastado mal eso significa que en los tres años que llevamos son más de diez millónes de euros claro mi pregunta es si el propio departamento de educación a través de la inspección de educación ha detectado

han hecho algo para recuperar ese dinero han sancionado a los centros que hayan gastado mal ese dinero o no lo hayan gastado han calculado ustedes

para verificar si eso se ha corregido eta zein izan da

por una parte está el dinero de los conciertos pero por otra parte tenemos otra cuestión pendiente también que también ha aparecido en los medios de comunicación que es el dinero procedente del programa de innovación tkgune de la lehendakaritza que gestiona también su departamento

que como digo gestiona la viceconsejería de formación profesional programa horren bitartez

ikastetxeek eta proiektu gehiago burutzen irabazi handiagoak zentroentzat entonces mi pregunta en esta segunda cuestión del dinero

de qué manera está su departamento actuando para conseguir garantizar un equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos educativos

y la actuación de colaboración con las pymes porque buscar

a través de ese programa una sobrefinanciación de los centros educativos

de la función educativa no es desde luego una buena forma tampoco de gestionar el dinero público en última instancia aquí

es de qué manera se financia la educación concertada usted lo sabe sabe la postura crítica de nuestro grupo sabíamos que es todo menos transparente

o no lo es muchas gracias eskerrik asko becerra jauna uriarte andrea zurea da hitza

jauna empezaré por aclarar varias cuestiones que usted ha citado que no son ciertas

dos temas diferentes que atañen los dos a la formación profesional pero que no son

lo que se trataba hoy el sindicato ela usted

y desde luego el análisis realizado no ha detectado ningún fraude ni habla de cantidades yo no sé de dónde saca usted nosotros no hemos dicho en absoluto

ni se haya cuantificado o sea que no sé de dónde se saca usted esa afirmación

zentro publikoetako arauaz aparte beste arau bat onartzeko aukera aztertzeko nahia se han compartido estas líneas de trabajo con algunas patronales con el compromiso de la adopción de las medidas correctoras que se consideren procedentes para mejorar los aspectos en el ámbito de la gestión de la formación de centros de trabajo y la seguridad toda esta información todos estos pasos son conocidos por los agentes implicados asimismo por parte del departamento se está trabajando

analizar la necesidad de actualizar los módulos económicos de financiación de los ciclos formativos de cara a las tareas preparatorias del anteproyecto de ley

de la implementación de las medidas correctoras que se consideren necesarias eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

barrio jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta consejeras

buenos días vamos a ver han sido tradicionales habituales las donaciones a instituciones

a hospitales desde siempre y ha habido benefactores de la misma manera que ha habido

en otros ámbitos de la asistencia fundamentalmente a las personas a los desfavorecidos a los enfermos y en ese sentido hemos visto

de esas actitudes y la sanidad pública vasca recientemente se ha beneficiado de aportaciones generosas

y por ello miles de personas de este país han podido mejorar sus expectativas de salud

por algún dirigente político en estas últimas semanas criticando esas donaciones y arremetiendo incluso insultando

que esas descalificaciones han sido perfectamente contestadas criticadas por la inmensa

y contestadas y muy bien por personas beneficiarias procesos médicos que han podido recibir gracias a las mismas gracias a esas donaciones procesos médicos de esas infraestructuras sanitarias que han podido recibir

o las han podido recibir en mejores condiciones han sido muchos además los testimonios de gratitud y de valoración de lo donado por parte de profesionales de la sanidad de sociedades médicas

de hematología recientemente en un comunicado conjunto los colegios profesionales y sus consejos en relación con estas cuestiones las asociaciones de pacientes

esta circunstancia y las autoridades sanitarias de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas

además la forma en que se ha realizado las donaciones y eso es un elemento muy importante ha sido enteramente y esencialmente colaborativa no ha dependido

que se dona sino se ha negociado se ha hablado con las autoridades sanitarias del conjunto de los sistemas españoles de salud

de los mismos y en ese sentido además de haber una donación de infraestructuras sanitarias además se ha hecho en ese carácter colaborativo y

en relación con lo donado incluso ha habido algún consejero de salud como el andaluz que ha pedido a la fundación

incluso en su valoración política a medio plazo

y le ha remitido una carta en ese sentido bueno nosotros no llegamos a tanto desde luego

y otras valoraciones en relación con lo que ha pasado y en relación con lo que puede seguir pasando y en qué

y que el análisis que hace el gobierno vasco además se ha dicho que

eso es una buena noticia porque después de las descalificaciones y los insultos la contestación ha sido pues voy a seguir manteniendo esta política de donaciones estas donaciones que benefician a la sociedad a los hombres y mujeres

pacientes en general a la sociedad íntimamente y así se ha pronunciado la fundación además tenemos que recordar que esa fundación

sus principales actuaciones también han estado en la educación es decir no solamente en esta tecnología sanitaria sino que las principales actuaciones

con miles de becas a estudiantes para estudiar

sus especialidades en estados unidos en canadá en reino unido

y sin olvidar las donaciones a entidades

que en ese sentido ha compartido también juntamente con las donaciones sanitarias en este caso es decir por eso es decir y viendo lo que ha pasado estos días y en esta campaña electoral yo creo que

y para seguir hablando y a la vista de que el departamento es beneficiario

a las que se ha asistido nos gustaría conocer esa valoración

la señora consejera sobre este tipo de donaciones y conocer su disposición a seguir colaborando con la fundación amancio ortega o con otros donantes privados no cabe duda

igual nos puede decir la señora consejera en relación con este tipo de donaciones y este tipo de actitudes generosas y altruistas

de las que podemos ser beneficiarios los vascos para finalizar nosotros creemos

grupo popular el partido popular cree que las donaciones de la fundación

son muy beneficiosas para la salud de los vascos y por el perfeccionamiento por la mejora de nuestro sistema sanitario y rechazamos rechazamos como lo han hecho la inmensa mayoría de la comunidad sanitaria

e insultos vertidos por políticos en campaña hacia quien además además de crear miles de empleos destina a la educación a la sanidad a los servicios sociales públicos todos ellos y esa actitud generalmente suele
merecer homenajes y no insultos muchas gracias eskerrik asko

legebiltzarkideok barrio jauna eguerdi on guztioi quisiera comenzar como ha señalado el propio señor barrio

en euskadi tenemos una larga tradición de legados testamentarios y donaciones al sistema sanitario de hecho estas donaciones cubrieron durante una época

para el mantenimiento de las diferentes organizaciones sanitarias sin ir más lejos el hospital universitario de basurto hospital que conozco bien es un ejemplo claro la importancia histórica de los legados y donaciones en el hospital de basurto es de tal magnitud que incluso su construcción se realizó gracias a las donaciones

y en ultramar estas variaban en el tipo de bien bienes inmuebles

o dinero en efectivo desde un edificio en salgua la grande cuba que basurto recibió como legado a finales de los años cincuenta hasta una chacra

de la calle colón de larreategui de bilbao que compartió el hospital al cincuenta por ciento con la santa casa de misericordia de bilbao o más recientemente el legado de otra mujer bilbaína de más de doscientos millónes de las antiguas pesetas

se realizó la instalación de los quirófanos del pabellón macua hoy en día la situación ha cambiado notablemente pero sigue habiendo personas que queriendo mostrar su agradecimiento al sistema sanitario público vasco y a sus profesionales siguen donando bienes y cantidades económicas

en los últimos años los hospitales vizcaínos han recibido casi uno millón de euros fruto de estas donaciones y legados donaciones

en beneficio de todas las personas en esta misma línea desde el departamento de salud y osakidetza siempre hemos agradecido la oportunidad que supuso para euskadi

de dos mil diecisiete firmaron el gobierno vasco y la fundación amancio

en vitoria gasteiz un acuerdo en el que ambas partes reafirmamos la apuesta por un servicio sanitario público de calidad para todas las personas la fundación amancio ortega decidió donar catorce millónes setecientos mil euros

para la compra de equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del cáncer en base a las necesidades

esta importante suma ha permitido a osakidetza a lo largo de los dos últimos años

en un menor tiempo del previsto presupuestariamente de cinco aceleradores lineales para radioterapia y de un mamógrafo equipos todos ellos

en euskadi hay que decir que desde la firma de este acuerdo de colaboración se están renovando aceleradores lineales en los hospitales universitarios de cruces basurto txagorritxu y donostia y ya lo he dicho estamos

de hecho el próximo mes de junio el nuevo acelerador de cruces ya estará en funcionamiento y a finales de año

lineal con unas características de ultimísima generación

teknologia aurreratuenak ere el plan de salud de euskadi dos mil trece dos mil veinte recoge los compromisos adquiridos por el gobierno vasco con la sociedad vasca para mejorar su salud aumentar su calidad de vida y reducir desigualdades precisamente esta misma semana se ha reunido el comité director del plan de salud con el lehendakari iñigo urkullu a la cabeza

que nueve de cada diez acciones u objetivos previstos en el plan ya se han iniciado o implantado en el marco de actuación de este plan de salud uno de los focos esta puesto en la atención de personas con cáncer porque a día de hoy

en euskadi el treinta coma ocho por ciento de las muertes anuales se deben a esta enfermedad aunque en las últimas décadas

así como el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y de tratamiento han aumentado notablemente las tasas de supervivencia y la calidad de vida de las personas con procesos oncológicos su elevada prevalencia así como el aumento en la complejidad de su diagnóstico y terapia hacen que para el departamento de salud

el cáncer constituya una prioridad indiscutible de ahí la importancia de este acuerdo de colaboración con la fundación amancio ortega firmado en dos mil diecisiete

mejorar en euskadi los recursos diagnósticos

destinados a las personas con estos procesos añadiré que actualmente el sistema sanitario público vasco cuenta con diez aceleradores lineales

y gracias al acuerdo suscrito con la fundación amancio ortega

esos aceleradores e invertir las partidas que hubiera sido necesario destinar a este fin a otras infraestructuras sanitarias euskadin

partiendo de la prioridad que nos hemos marcado de abordar y atacar con todos los recursos la primera causa de muerte en euskadi

valoramos positivamente el acuerdo de colaboración que firmamos y estamos abiertos a analizar y explorar todas aquellas vías que consideremos pueden beneficiar

el derecho de cada persona a pensar lo que quiera a este respecto pero hay que decir que no estamos ante ningún caso excepcional ni poco habitual al comienzo de mi intervención me he referido a la larga tradición de legados testamentarios y donaciones al sistema sanitario que hemos vivido en euskadi pero hoy en día también seguimos teniendo ejemplos diarios de convocatorias

a becas de investigación a becas de ayudas a la innovación recientemente firmamos un convenio con la bbk para seguir potenciando la

la kutxa durante años ha respaldado económicamente y va a seguir haciéndolo a onkologikoa de donosti y en sociedades tan avanzadas como la sueca se dan casos similares ikea por ejemplo es la principal empresa benefactora del instituto de investigación karolinska beraz

datos en relación con otros donantes y con cantidades que tienen relevancia y que llevan a que compartamos el hecho de que ese esfuerzo

de benefactores de donantes de personas generosas o altruistas o que deciden dárselo en este caso a la sanidad

ha sido tradicional y habitual pero que se sigue haciendo y del que nos beneficiamos todos y además lo más importante de todo queda claro en las explicaciones y por eso lo procedente de la pregunta en relación con las donaciones es decir

cinco forman parte de la donación en relación con las necesidades es que es impresionante la cantidad en relación con la tecnología de la que disponemos o sea que es un apoyo

apoyo esencial importantísimo a nuestro plan oncológico

y a que se cumplan sus objetivos nos ha explicado bien la importancia desde luego

esta donación va a hacer que se cumplan los objetivos de nuestro plan de salud y

o sea miles de beneficiarios que en condiciones normales no lo serían de esa manera o sea que en ese sentido hay que darse cuenta de la importancia

y de lo que ha supuesto para nuestra sanidad y por eso mismo nosotros

además que la sociedad vasca sea agradecida y traeremos una moción traeremos una moción para que hablemos entre los grupos

para que seamos agradecidos para que valoremos lo que tenemos y valoremos lo que recibimos en ese sentido es

y desde luego queremos agradecer públicamente y como pueblo

puedan seguir manteniéndose en el tiempo y que lo haga de esa manera

no se pueden criticar cosas por criticar no se puede insultar por insultar no se puede insultar a quien

hace que tus objetivos de salud se cumplan a que tus

se lleven a cabo se puedan llevar a cabo insultar criticar

es una cuestión lamentable y nosotros debatiremos de eso en un próximo pleno muchas gracias

bera bere familia eta lagunak quisiera aprovechar

o contra cualquier otra enfermedad la tecnología es fundamental pero no lo es todo

y los profesionales de la organización la renovación de equipos tecnológicos y la capacidad de los y las profesionales

la mejor de las respuestas a las demandas de la sociedad de ahí la importancia de la coordinación entre recursos materiales y profesionales

entre distintas instituciones para seguir avanzando etcétera en el caso del sistema sanitario vasco llevamos años siendo la comunidad autónoma que más dinero dedica a la salud e invierte por cápita

euros en el momento actual este año dos mil diecinueve estamos gestionando un presupuesto

una tercera parte del conjunto del presupuesto del gobierno vasco todos y todas sabemos que es un presupuesto que tiene límites tres mil ochocientos millónes que hay que respetar y gestionar

qué nos permiten las donaciones los convenios los legados económicos que recibimos pues en general nos permiten llevar a cambio lo que realizamos con ellas inversiones que estando ya previstas de una manera más rápida podemos destinar

a otras necesidades lo que quiero decir con ello es que tenemos un presupuesto y toda aportación necesidades en el sistema es cierto y se utiliza todo aquello que es donado ya digo por fundación amancio ortega y otras fundaciones tanto para aspectos existenciales diagnósticos terapéuticos investigación

eguerdi on guztioi coincido plenamente con usted señora otamendi la preocupación por todos los accidentes laborales y quiero comenzar esta intervención mostrando

de los fallecidos en accidente laboral todos los accidentes laborales suponen un fracaso de la sociedad pero cuando el desenlace

persona afloran las emociones y las estadísticas y las estrategias se quedan en un segundo plano pero esto no es más que una primera reacción

de que lo que nos queda es seguir trabajando para procurar que no vuelvan a ocurrir en varias ocasiones hemos conversado usted y yo sobre este problema y hoy como en otras ocasiones tengo que reiterarle que la vía es seguir utilizando los recursos

laborales osalan y la inspección de trabajo cada vez que se produce un accidente la primera acción es la investigación

los datos necesarios con las que sentar las bases para que las circunstancias que han provocado un accidente no vuelvan a producirse

se dedica la inspección de trabajo y osalan para ello técnicos y técnicas de osalan e inspectores e inspectoras

inmediatamente en el lugar donde ha ocurrido un accidente mortal otra medida que aplicamos con absoluta precisión es no ocultar jamás los datos de siniestralidad hayan tenido el desenlace que hayan tenido a unos les pueden parecer más o menos graves pero para todos son mejorables la transparencia es un elemento más de la prevención de la salud laboral que ayuda a la concienciación de la sociedad en su conjunto

justifiquen que la siniestralidad es inherente al trabajo

y no los podemos considerar como factor que va unido a la producción que va unido al trabajo soy consciente que cada día tenemos que mejorar los medios que tenemos incrementar nuestros recursos materiales y por eso hemos aumentado la plantilla de técnicos de prevención en esta legislatura que completaremos en dos meses con dos más

lo mismo puede indicar de la inspección de trabajo que estoy comprometida a reforzar y que nunca ha tenido tantos inspectores y subinspectores como a día de hoy además hemos creado seis plazas

a la mayor brevedad posible estas son señora otamendi algunas de las medidas que hemos aplicado y que están ayudando a mejorar la situación
que queda mucho trecho por recorrer pero tengo el convencimiento de que vamos por el buen camino eskerrik asko

otra más es la formación de los delegados y delegadas de prevención

de todos los agentes sociales junto con el gobierno y en este sentido decir que en el seno de la mesa de diálogo social se ha creado un grupo de trabajo específico de seguridad y salud laboral es necesario activar la negociación colectiva y plantear las cuestiones de prevención como primordiales

que se contemplan en los obligatorios planes de prevenciones en cada una de las empresas

debe integrarse en su sistema general de gestión como una herramienta fundamental para cumplir con su obligación legal de proteger a los trabajadores y trabajadoras

colaboración de todas las partes implicadas cumplimiento estricto de la ley

que en veintiséis años de existencia de osalan se ha reducido a la mitad eskerrik asko eskerrik asko